buenas tardes a todas y a todos señor lehendakari buenas tardes hace quince días interpelé al lehendakari para que pudiera explicar en sede parlamentaria y dar cuenta de algunas de sus actuaciones

y convivencia que lejos de procurar la deslegitimación del terrorismo la defensa de las víctimas o la defensa

sobre nuestra historia reciente lo cierto es que procuraban y procuran enredarlo todo acercarse a batasuna y en última instancia defender

político lo cierto es que finalmente el lehendakari no respondió y en su lugar lo hizo el portavoz del gobierno vasco lo cierto es que el señor

absolutamente nada de lo que nosotros le preguntamos y lo cierto es que como consecuencia de esa respuesta hemos decidido registrar finalmente esta moción que

la idea que tenemos con esta moción es censurar las últimas decisiones las últimas actuaciones promovidas por la secretaría de paz y de convivencia

de este gobierno en lo que se refiere a las víctimas del terrorismo y además de censurar protestar y decir que no estamos de acuerdo con esas decisiones y esas actuaciones procurar también incluir una en positivo y que tiene relación con la celebración institucional del día de la memoria lo cierto es que yo en aquella interpelación planteé algunos temas en concreto la reunión mantenida

con determinados alcaldes de determinadas ciudades de euskadi su pretensión también en relación a

víctimas del terrorismo con otras víctimas también su listado elaborado de víctimas homenajeables y la celebración del día de la memoria estos son los asuntos que yo traté

interpelación y lo cierto es que nos pareció y nos sigue pareciendo que la respuesta del gobierno fue ciertamente lamentable de ahí la moción

todas aquellas actuaciones todas aquellas decisiones que ponga en marcha el gobierno vasco que nosotros consideremos que no van en la línea adecuada

el terrorismo y para defender a las víctimas del terrorismo nosotros vamos a denunciarlas en sede parlamentaria es lo que hemos venido haciendo en el pasado lo que hacemos hoy y lo que seguiremos haciendo en el futuro esa es nuestra forma de colaborar en la construcción de la convivencia

a las víctimas del terrorismo esa es nuestra manera de intentar impedir que no haya impunidad en euskadi esa es la manera que tenemos nosotros de defender la justicia la verdad y la memoria de las víctimas del terrorismo en relación a la reunión

por el lehendakari con alcaldes del partido nacionalista vasco del partido socialista de euskadi y de eh bildu para supuestamente impulsar la realización de homenajes a víctimas de eta y a supuestas víctimas de abusos policiales yo al lehendakari le planteé básicamente dos cuestiones y le pedí explicaciones por básicamente dos cuestiones

las razones por las cuales decidió no invitar a esa reunión a un partido como el partido popular que es uno de los partidos políticos que durante los últimos tiempos más ha sufrido los ataques de eta

pedirle explicaciones por su pretensión que se mantiene en el tiempo de mezclar a las víctimas del terrorismo con otras víctimas

con otras supuestas víctimas lo cierto es que el gobierno vasco en lugar de organizar homenajes en todos los lugares donde hubo víctimas de eta

para confundirlo todo contentar a batasuna y defender la teoría del conflicto político y nosotros no estamos en absoluto de acuerdo con esta pretensión vamos a hacer todo lo posible para que esto no se pueda llevar a cabo creo que es sencillo de entender y me refiero en concreto a estas dos decisiones tomadas por la secretaría de paz y de convivencia o por el propio lehendakari

y dejar fuera al partido popular y la pretensión del gobierno vasco de mantener la línea de querer mezclar a las víctimas del terrorismo

o con otras víctimas lo cierto es que si echamos un vistazo al listado que se incluye dentro de lo que se ha llamado

a la vida en el caso vasco lo cierto es que podemos concluir que este listado es un auténtico escándalo presenta a veintiuno etarras como víctimas incluye algunos casos de suicidios y media docena de fallecidos por acepciones de cáncer o de otras dolencias los autores del informe han hecho caso omiso a la existencia de resoluciones judiciales que han eximido de responsabilidad a las fuerzas de seguridad del estado no solo se ignoran sino que voluntariamente se ocultan fallos de la justicia española de la francesa

y es por lo tanto un auténtico escándalo además de a veintiuno etarras el gobierno vasco su gobierno señor lehendakari propone tratar como víctimas a trabajadores muertos en protestas sindicales y a fallecidos con cargas de la ertzaintza y la policía

y archivados por la justicia incluso por tribunales franceses se incluye a personas que fallecieron por causas naturales y enfermedades varias se pone en duda determinadas actuaciones de la ertzaintza que atutxa en su momento o el propio ibarretxe defendieron

se alude a fallecimientos que se registraron dos años después de una actuación policial entre otros algo absolutamente escandaloso y es algo que hemos denunciado algunos partidos de la oposición en concreto el partido popular y el partido socialista de euskadi y también

erkoreka en aquella interpelación no aclaró absolutamente nada y no explicó las razones por las cuales se configura de ese modo ese listado de

homenajeables ciertamente pensamos que hay que ser muy irresponsable o tener muy malas intenciones para presentar un listado semejante un listado por cierto que ha indignado a la mayoría de las víctimas del terrorismo un listado que no puede ser entendido por los grupos democráticos de este parlamento ciertamente como digo hay que tener muy malas intenciones o ser muy irresponsable para presentar un listado con esas características por lo tanto con esta moción lo que queremos es censurar estas actuaciones que se mantienen demasiado en el tiempo mantenidas e impulsadas por este gobierno vasco

queremos volver a decir que determinadas actuaciones y en concreto esas actuaciones lo que hacen es fomentar la teoría del conflicto político por mucho que el señor lehendakari repita por activa y por pasiva que no pretende tal cosa

lo cierto es que en nuestra opinión esas actuaciones fomentan la teoría del conflicto político y dan un balón de oxigeno a eh bildu ya digo upyd quien realiza solamente estos planteamientos son otros partidos políticos los que en los últimos días han venido a decir cosas parecidas esa es la razón por lo tanto

de nuestra moción únicamente el grupo popular y el grupo socialista han presentado enmiendas el grupo socialista no quiere firmar ninguna transaccional en relación a este asunto

ni con upyd evidentemente está en su derecho y defenderá su propia enmienda nosotros sí hemos firmado una transaccional con el grupo popular consta

y lo que plantea es lo siguiente pretendemos que este parlamento constate el fracaso del plan de paz y convivencia del gobierno vasco así como los programas y planes

esto ya fue defendido por parte del grupo popular del grupo socialista y del grupo upyd hace no demasiado tiempo hace algunos meses antes del verano en el segundo punto lo que proponemos es que este parlamento exija al gobierno vasco que abandone definitivamente su propósito de mezclar

puesto que esa estrategia pretende avalar las tesis del conflicto político y beneficia las posiciones de quienes siguen sin condenar a eta es algo además gratuito que no tiene ningún tipo de justificación proponemos también que este parlamento deplore el informe elaborado por la secretaría general de paz y convivencia

en el caso vasco y que censure al lehendakari por este inaceptable y tendencioso informe que le inste a que ordene su corrección y rectificación

en este sentido y le exija la remodelación también completa de la secretaría general

por parte de la secretaría general de paz y convivencia hace no demasiado tiempo conocimos también un informe de esa secretaría en relación a los crímenes cometidos por eta pendientes de resolución un informe que contenía innumerables errores reconocidos por el propio lehendakari

esto tiene o puede tener una sola explicación que o no se trabaja bien o no se es suficientemente competente o se tiene muy mala idea o muy malas intenciones en el cuarto punto lo que proponemos es que este parlamento inste al gobierno vasco a impulsar todas las acciones que sean necesarias para que los municipios vascos o en su lugar el propio gobierno vasco homenajeen a las víctimas del terrorismo en todos aquellos municipios donde eta asesinó

de donde eran originarias sus víctimas ciertamente estamos en el año dos mil quince y todavía no hemos conseguido un objetivo que debería ser compartido por todos los partidos políticos democráticos de este parlamento que allí donde eta asesinó se pueda homenajear como merecen a las diferentes víctimas del terrorismo ni esto hemos sido capaces de hacer ni siquiera

el gobierno vasco podría hacerlo pero no quiere lo que plantea básicamente es que este es un asunto de competencia municipal y nosotros pensamos que este no puede ser un asunto entendido como tema municipal sino que va

para llevar a cabo esos homenajes y finalmente un quinto punto en el que proponemos que este parlamento inste al gobierno vasco y se comprometa él mismo a impulsar un homenaje institucional a las víctimas del terrorismo el próximo día diez de noviembre

el sentido original del día de la memoria únicamente en una sola ocasión hemos sido capaces de celebrar ese día de la memoria el día para homenajear como se merecen a las víctimas del terrorismo a partir del siguiente año lo cierto es que esto ya se cambió el sentido del día de la memoria y lo que nosotros venimos a decir es algo muy sencillo pensamos que las víctimas del terrorismo de eta merecen un homenaje específico y qué mejor día que ese día de la memoria esta es por lo tanto la transaccional que he firmado con el grupo popular

su buena voluntad su disposición y sus aportaciones para firmar esta transaccional y defenderla en este pleno

muchas gracias señora presidenta buenas tardes lehendakari señoras y señores parlamentarios

el señor maneiro ha hecho una presentación una exposición extensa de lo que es nuestra iniciativa yo no seré tan largo pero sí que diré que básicamente estábamos

también estamos de acuerdo con la enmienda de totalidad que presenta el grupo socialista

a la proposición inicial dos enmiendas de sustitución y de adición al texto original no han sido asumidas pues entonces estamos de acuerdo con el texto que hemos firmado

votaremos con posterioridad al debate el trabajo de la secretaría

y convivencia del gobierno vasco es lamentable y distorsionador no es objetivo ni ecuánime

es una máquina de embutir informes nocivos

es relevante pero por lo equivocado y por lo pernicioso es absolutamente necesaria

reorientación una nueva orientación en esa sección del gobierno en esa secretaría el informe aludido en la iniciativa no puede no debe contener propuestas proyectos de homenajes a criminales

es inaudito que el gobierno vasco proponga homenajear a etarras

de una banda terrorista este informe

desde la más absoluta equidistancia y desde la exaltación

del conflicto además este documento es uno más en una larga lista de desequilibrios de miradas hacia otro lado

esos desequilibrios esas miradas esos olvidos miradas hacia otro lado tenemos que recordar también en ese sentido que es el trabajo de la secretaría que hace el ocho de mayo del dos mil catorce hace año y medio

el señor maneiro recordaba otros acuerdos que hemos tenido más recientemente pero yo tengo que recordar que también firmábamos una transacción en aquel momento

la mayoría nacionalista el tándem que hacen en todos estos temas el partido nacionalista vasco y bildu y decíamos en aquel momento que ya lo considerábamos algunos grupos aquí que el parlamento

un nuevo equipo compuesto por personas reconocidas por su trayectoria de apoyo a víctimas del terrorismo que sustituya a quienes conforma la actual secretaría general de paz y convivencia y que tenga como objetivos fundamentales garantizar la reparación la memoria la dignidad de las víctimas del terrorismo contar

como requieren y merecen hacer justicia impedir la impunidad de los criminales elaborar y consensuar con los partidos políticos democráticos un nuevo plan

defendidas por eta y que desarrolla acciones transversales que sustenten y defiendan los principios democráticos y la convivencia

y en lo que ha perseverado la secretaría de paz y convivencia es en todo lo contrario bien

no me voy a extender mucho más el señor maneiro ha repasado la enmienda de

desde nuestro punto de vista son inequívocos el primero la constatación absoluta del fracaso del plan de paz y convivencia cómo fue concebido cómo fue impulsado en un primer momento en la acción del gobierno de este gobierno y constatar ese fracaso nosotros lo hacemos y lo hemos trasladado a sus señorías a través de esta enmienda de transacción exigir al gobierno vasco que abandone definitivamente su propósito de mezclar víctimas de hacerlo de esa manera

hemos querido reconocer a todas pero hacerlas de la manera que hay que hacerlas con el reconocimiento que todas y cada una se merecen no en ese magma

de mezclar como lo hace y que se pone de manifiesto en el punto dos

el informe del gobierno vasco es y lo queremos constatar en esta enmienda transacción

retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la vida en el caso vasco

no puede ser no es objetivo y no puede ser y es censurable y en ese sentido censuramos al propio lehendakari desde luego por ese inaceptable y tendencioso informe está claro lo lamentamos

que ordene desde luego su corrección y su rectificación atendiendo a los criterios que las asociaciones de víctimas del terrorismo han hecho públicas en relación con las necesidades de esos homenajes

y desde luego exigir en ese punto la remodelación de la secretaría de paz y convivencia está bien claro que

que tienen que ser impulsar acciones necesarias en los municipios vascos

seguimos instando desde luego desde esta enmienda de transacción como también lo hacemos a que este propio parlamento

recuperando el sentido original del día de la memoria eso es una cuestión que nos ha ido sorprendiendo en los últimos años y que lamentamos desde luego y que nosotros exigimos

para concluir señorías es que empleamos mucho tiempo en este parlamento en hablar del señor fernández y de su labor en la secretaría y todo ese tiempo orientado a la insatisfacción

al desaliento es triste eso es triste es una lástima que el señor lehendakari no haya acertado en esta cuestión es una legislatura señor urkullu perdida

al mundo que rodea eta muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria pastor jauna zurea da hitza

gracias presidenta bien vuelve a este pleno un asunto que no debiera ser objeto de controversia

porque nació con un defecto que es la falta del consenso previo y sin la claridad de conceptos que requieren proyectos de esa naturaleza y envergadura algo que le hicimos constar por escrito por cierto a la propia secretaría de paz y convivencia y efectivamente me estoy refiriendo a esto al plan de paz y convivencia aprobado en solitario por el gobierno

y no precisamente para bien el asunto de hoy viene motivado por la desafortunada gestación de los llamados retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la vida

y el pasado cuatro de septiembre el propio señor fernández y el lehendakari entregaron solemnemente en bilbao a los alcaldes de ciento treinta municipios de euskadi donde se habían producido víctimas mortales se trata como figura en el encabezado del documento

leo textualmente ofrecido a los ayuntamientos para facilitar el impulso de actuaciones memoriales y de reconocimiento de las víctimas

propiciar actos de recuerdo o de homenaje el problema es que ese documento que es oficial porque está elaborado por el gobierno vasco

y que se entrega formalmente a unas instituciones públicas está a nuestro entender lleno de inexactitudes y genera confusión sitúa en el mismo plano a unas víctimas y a otras

y han sido reconocidas como tales pero que en absoluto entendemos deben ser homenajeadas por ser a su vez victimarios también y en algún caso

junto a las personas que fueron víctimas de organizaciones terroristas las distintas ramas de eta los grupos de extrema derecha los grupos parapoliciales y a fallecidos por actuaciones de las fuerzas de seguridad

supuestos de vulneraciones del derecho a la vida de autoría confusa y otros así como textualmente dice otros casos que necesitan de mayor contraste pues señores del gobierno vasco si necesitan de mayor contraste hubiera sido mucho más oportuno no haberlos incluido

el grupo socialista y así se recoge en una pregunta que hemos presentado al lehendakari sobre este asunto hemos constatado que en estos tres últimos apartados de los retratos municipales figuran al menos

no incluidos en la ley de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo del dos mil ocho ni en el decreto sobre víctimas de abusos policiales y que fallecieron en enfrentamientos con la policía

en algún caso muertes por enfermedad por suicidio etcétera por otro lado se han incluido también casos dudosos o ya analizados con resultado negativo

en el periodo mil novecientos sesenta mil novecientos setenta y ocho y esto

ni responsable y probablemente tampoco casual los socialistas vascos ya advertimos de este desenfoque deliberado cuando se presentaron los retratos municipales de las víctimas

que entendíamos que se estaba desnaturalizando el mapa de la memoria

y que tenía una finalidad muy clara y asumida por todos hasta aquel momento situar y recordar en la geografía vasca los lugares donde el terrorismo el de eta principalmente y los otros terrorismos causaron víctimas mortales para así construir una memoria clara de lo que ha ocurrido en nuestro país

que se desdibuja con unos retratos municipales que meten en el mismo nicho a muertos de distinta naturaleza y en no pocos casos a fallecidos por una motivación política más que dudosa como poco porque el cáncer o la carretera que se sepa no entienden de ideologías esas actuaciones no son nuevas

y su secuela interminable de planes subplanes programas estudios e iniciativas varias con nombres narcotizantes por eso porque son continuas y sucesivas

sino que obedecen a un propósito y no puede ser otro que el de mezclarlo todo

a la que más específicamente se ha desarrollado en euskadi el terrorismo de eta y los terrorismos que intentaron combatirlo criminalmente es decir el terrorismo que más ha matado

y más apoyo social ha recibido el propósito de dar soporte a la tesis de que ha habido una sucesión de conflictos impuestos al pueblo vasco que arrancarían

y eso entendemos que no puede ser admitido porque supondría

de toda responsabilidad a quienes con una euskadi autogobernada y democrática mataron y amenazaron con muchísima mayor virulencia que durante la dictadura franquista

incluso ha hecho autocrítica y propósito de enmienda por el abandono que sufrieron en el pasado las de eta

el problema es que eso que dice usted en las grandes palabras no es lo que luego hace su gobierno

y en muchas ocasiones incluso lo contrario de lo que se proclama los socialistas consideramos que todas las víctimas de la violencia todas deben ser reconocidas y atendidas pero una política de memoria y de eso estamos hablando aquí digna de tal nombre no puede mezclarlo todo como se viene haciendo una memoria con la que todos estén cómodos que parece ser lo que se buscaba con esos retratos municipales las víctimas

no solo no es posible sino que además es injusto y absolutamente falso mi grupo

comparte con usted alguna de las valoraciones que expone en la moción que ha presentado pero consideramos que no nos podemos quedar solo en el mero reproche sino que debemos intentar avanzar

revisando el pasado sin tergiversaciones pero desde luego con la vista puesta en un futuro mejor por eso vamos a defender la enmienda a la totalidad que hemos presentado

puede poner objeciones a lo que dice la necesidad de trabajar desde el consenso el rigor y la discreción para construir nuestra convivencia desde el principio básico de que ninguna causa política puede situarse por encima de los derechos humanos y desde el reconocimiento de la injusticia de la violencia y del daño causado

merecedoras todas ellas del derecho a la verdad la justicia y la reparación el compromiso de las instituciones con el reconocimiento

de todas las víctimas de bandas terroristas y excesos policiales que así sean reconocidas sin que ninguna de dichas actuaciones pueda ser utilizada para hacer apología del terrorismo o humillar a quienes lo sufrieron y la petición al gobierno vasco a su secretaría de paz y convivencia

para impedir que las víctimas del terrorismo y excesos policiales así reconocidas se mezclen con casos no contrastados o cuando menos dudosos y para que en cualquier caso

vaya acompañado de la deslegitimación y condena expresa del uso de la violencia y no presentamos esta enmienda con el ánimo ni de polemizar ni de crear discusiones estériles sobre un tema que nos parece lo suficientemente serio para hacerlo así pero creo que ustedes deberían ser capaces de hacer al menos algo de autocrítica

en esta materia y que a nosotros sinceramente nos parece que no se corresponde con el objetivo declarado de esta secretaría y de las políticas de memoria

esaten dudan moduan azpimarratu nahi ditut hoy podíamos haber estado aquí tratando otra moción

también traía consigo aparejadas otras voluntades otras actitudes otro tono y que por lo tal

y sin embargo estamos otra vez nuevamente discutiendo una moción presentada por el señor maneiro una discusión de más de lo mismo un portazo precisamente a la posibilidad de hacer algo distinto una moción que

de inicio a la casilla de salida una moción para retrotraernos a esos espacios de confort a esos espacios de

para retrotraernos a esa trinchera discursiva al calor de nuestras certezas pero que no nos sirve absolutamente para nada más no es este el método y además pensamos que este debate no es absolutamente nada eficaz

no creo que después de este debate vaya a haber ninguna víctima que se sienta más reconocida que se sienta más reparada sea del signo que sea no creo que haya ninguna víctima que crea que hoy hay más empatía por parte de este parlamento hacia ella

guztiekin beraz independientemente de que no vayamos a entrar en la estrategia

de la manipulación de la tergiversación de los oídos sordos a las explicaciones que se piden y se le dan porque el señor maneiro aplica la máxima de que la realidad no te estropee un buen titular o en este caso un buen prejuicio y a usted le da igual lo que responda el lehendakari o quien sea que usted independientemente de lo que le responda

que ha dicho que nuestra obsesión es acercarnos a batasuna cuando batasuna no existe ya desde hace un montón de años pero ustedes como le decía a un compañero esta mañana y también se lo había dicho en otra ocasión como don erre que erre en esto pero es que

y no solo nosotros yo creo que la sociedad en general que lo tiene ya no a upyd por supuesto sino al monotema que usted

hacer que no se olvide y que se lea correctamente pero no por el camino que usted lo hace señor maneiro pero es que no estamos de acuerdo con ninguno de los puntos de la moción y por eso vamos a votar en contra primero porque es imposible que constatemos el fracaso del plan de paz cuando el plan de paz no ha fracasado

cuando no es verdad la afirmación cuando el plan de paz está funcionando todos sus objetivos

están funcionando están en marcha están siendo evaluadas satisfactoriamente muchos de ellos por los propios usuarios por las propias víctimas y por los evaluadores externos eso sí si la evaluación no nos gusta nos cargamos a los evaluadores

da igual que la realidad no nos estropee un buen titular señor maneiro el parlamento dice usted

es que no es verdad por mucho que usted continuamente insista e insista en sus prejuicios no es verdad y por lo tanto no podemos votar a favor

y la mayoría política de esta cámara está defendiendo la igualdad de derechos

vulneraciones de derechos humanos iguales y la igualdad de trato para todas las víctimas la filosofía que inspira el plan de paz y no es solamente una cuestión de filosofía

desde hace ya unos meses hay un mandato legal y no se les olvide señor pastor que no es un asunto que en el dos mil nueve funcionase de una manera hay un mandato legal aprobado a instancias del grupo socialista y del grupo nacionalista vasco

mandatado creado por este parlamento para impulsar coordinar y planificar las políticas de memoria en este país

de a qué violencia se está refiriendo a qué victimarios se está refiriendo a qué víctimas se está refiriendo y qué trato se tiene que dar a todas ellas es que no podemos mirar a otro lado tenemos un mandato legal que hemos impulsado ustedes y nosotros y a ese mandato legal se atienen el plan de paz y convivencia y a ese mandato legal se atienen todas las políticas

no es verdad primero que sea ninguna herramienta para el reconocimiento de las víctimas porque no se trata de un instrumento jurídico para el reconocimiento de víctimas

en manos de los ayuntamientos para impulsar proyectos memoriales mire estamos haciendo

lo mismo que pactamos con ustedes

estamos haciendo lo mismo estamos avanzando en aquellos consensos de los que usted no sé por qué se sale en su discurso porque luego en realidad a la hora de concretarlo como por ejemplo el instrumento más potente que puede salir de un parlamento que es una ley estamos de acuerdo en todo

aprobar una ley por lo tanto no se ha inventado nada

a miembros de eta es rotundamente falso y usted puede bajar aquí las veces que quiera

señor maneiro y el gobierno vasco ya está haciendo lo que se le pide en el cuarto punto ya lo está haciendo desde la legislatura anterior

criterios que se hizo en la legislatura anterior con los mismos criterios que según se iban incorporando reconocimientos de víctimas se iban incorporando a las políticas de memoria a las políticas de memoria por lo tanto no me hable de que mezclamos víctimas por cierto víctimas que ya están mezcladas también

le haya temblado para nada ni el pulso ni el ojo tan siquiera ante esa situación por lo tanto que el gobierno sepa claramente que estamos

con la secretaría de paz y convivencia cuenta con todo el apoyo de mi grupo

el falseamiento de la realidad que está haciendo el señor maneiro y no vamos a participar en esa forma de proceder en política la verdad es que

nos ofrece tres puntos el tercero de los puntos no lo compartimos en absoluto

y por lo tanto no podemos apoyarlo en los dos primeros en realidad no tendríamos ningún inconveniente es que lo hemos

no solamente en expresiones lo hemos aprobado ya lo hemos aprobado ya tantas veces

es necesario volver a hacerlo es necesario volver a aprobar lo que ya hemos aprobado no es banalizarlo

una declaración un compromiso solemne sino un tótem

venga la conveniencia yo sinceramente no sé cómo se puede dar cumplimiento al primero de sus puntos con el que estoy absolutamente de acuerdo en el sentido de

la necesidad de trabajar desde el consenso el rigor y la discreción en la tarea a construir

si uno no participa en los instrumentos creados para ellos como se puede trabajar como lo hemos hecho hasta ahora en legislaturas anteriores y en años anteriores desde el rigor desde el consenso y desde la discreción

si despreciamos si no acudimos al instrumento que todos coincidimos que es un instrumento necesario que es el de la ponencia que mantiene al abrigo del rifi rafe diario

las políticas de memoria y la convivencia mire señor pastor dos no acuerdan si uno no quiere y cada uno ve efectivamente la historia desde su punto de vista

que llevo ya unos años en esto sinceramente creo

y es posible que hayamos cometido algún fallo no voy a negar porque

que no creo que ustedes se estén comportando con este gobierno con la misma lealtad que mi grupo se comportó con su gobierno

de convivencia y de memoria y a mí solo me gustaría que recuperemos esa forma de trabajar y les invito a que

tiene usted para todos para todos menos para eh bildu casualmente señor iturrate ya sabemos que el grupo nacionalistas vascos apoya al gobierno enhorabuena el partido nacionalista vasco apoya al gobierno del partido nacionalista vasco ya lo sabíamos ahora bien quien más apoya al gobierno

deslegitimación del terrorismo y defensa de las víctimas del terrorismo quien más defiende al gobierno

atacando a un servidor tratando de trasladar la idea de que yo

defendiendo cosas absurdas pero realmente el que está solo aunque sea un grupo mayor es el partido nacionalista vasco porque habiendo escuchado a los representantes del partido popular y del partido socialista de euskadi lo cierto es que ambos grupos junto con un servidor estamos permanentemente criticando determinadas

plan de paz y convivencia defensa de las víctimas del terrorismo

esa es la realidad quien más les apoya a ustedes obsesiones qué obsesiones monotema qué monotema monotemático un servidor

o usted que siempre que baja a la tribuna habla de estos asuntos

seré yo es decir traigo este asunto y traigo otros muchos asuntos de hecho intervengo en prácticamente en todos los temas

muy importante para upyd y no vamos a abandonarlo vamos a seguir reivindicando los principios democráticos que siempre hemos defendido por lo tanto

en absoluto se trata de defender a las víctimas del terrorismo y decir algunas cosas que por cierto parece que otros grupos también comparten señor iturrate

supongo que el partido popular y el partido socialista de euskadi escuchan ustedes sus intervenciones escuchan ustedes sus reivindicaciones

en muchos temas al menos será que en fin algún tipo de autocrítica deberán realizar ustedes ustedes hablan de las reivindicaciones de las víctimas del terrorismo a qué víctimas del terrorismo se refieren ustedes a aquellas víctimas del terrorismo que comparten algunas ideas del gobierno vasco ese grupo minoritario perfectamente respetable pero minoritario en definitiva

escuchan ustedes a covite que es la asociación mayoritaria de víctimas del terrorismo porque covite efectivamente como otros grupos de esta cámara ha sido una asociación muy crítica con todas las actuaciones llevadas a cabo en este asunto con el gobierno vasco y efectivamente han hablado

y han denunciado el propósito de este gobierno

de defender la teoría del conflicto político esto solo lo dice upyd no lo dicen también los partidos políticos que han sufrido a eta lo dicen también la mayoría de las víctimas por lo tanto en fin algo de autocrítica tendrán que hacer ustedes usted

qué apoyos tiene este plan de paz y convivencia quién lo apoya

lo apoya el partido popular yo tampoco lo apoyo con quién buscan ustedes alianzas

efectivamente esto de que se mezcle a las víctimas de eta con otras víctimas o con las víctimas de abusos policiales en fin es una idea peregrina de un servidor se lo están diciendo otros grupos parlamentarios se lo están diciendo los grupos que más han sufrido los embates de eta algo de razón tendrán porque tampoco les escuchan ustedes a ellos

elaborado por el gobierno vasco y por el señor fernández es perfecto pues ha sido duramente criticado por las asociaciones de víctimas ha sido criticado por los diferentes grupos parlamentarios no admiten ustedes ningún tipo de crítica están solos por lo tanto solo ustedes defienden planteamientos y dice que ustedes están impulsando homenajes a las víctimas del terrorismo no lo que están pretendiendo hacer es mezclar unas víctimas con otras y no me dice nada

idea y nuestra propuesta de conmemorar el próximo día diez de noviembre un homenaje a las víctimas del terrorismo tal como se hizo el primer año creo que las víctimas del terrorismo merecen al menos un día al año de homenaje ni siquiera eso acepta en definitiva el gobierno vasco

en fin habla de más de lo mismo de posiciones de inicio de espacio de confort

discursiva de no vale para nada y efectivamente no es eficaz evidentemente en otros planteamientos no son válidos para ustedes nuestros planteamientos se basan en contar la verdad en deslegitimar a eta en defender a las víctimas del terrorismo y en defender la justicia y por lo tanto es lógico que ustedes no compartan esos
principios para terminar amaitzen joan maneiro jauna se habla también de ponencia

y para deslegitimar el terrorismo no hay que inventarse nada no hay que retorcer las palabras

un ápice a los servicios auxiliares de eta no hay que querer parecer simpático ni mucho menos traicionarse los principios democráticos que uno siempre ha defendido lo que hay que hacer en definitiva es defender la ley defender el estado de derecho y aplicar

a las víctimas del terrorismo y escuchar más a los grupos de la oposición justo lo que este lehendakari y este

gracias presidenta brevemente también para decir primero
al señor arzuaga que como siempre su discurso se mueve en el sarcasmo

usted no se desmarca de la violencia de eta y viene aquí hablando de lo que empatiza

a las víctimas es decir de qué declaraciones lo hacen o no lo hacen

desacreditado de raíz todo su discurso permanentemente en esta cuestión ya se lo he dicho muchas veces el señor iturrate pues el informe

del pnv para encajar acuerdos con bildu una vez más y van más de veinte en esta legislatura

y desde luego por supuesto que busca el homenaje a quien no debe

no lo dice el partido popular u otros grupos eso lo ha dicho los medios de comunicación y lo ha dicho las víctimas y lo ha dicho

no tiene ningún sentido que el lehendakari haga en junio un discurso orientado a las víctimas del terrorismo en los términos en los que lo hizo y en los que realizó y a las pocas semanas quiera desde luego

de homenaje a responsables del sufrimiento de esas víctimas a nosotros no nos importa tanto como al señor maneiro que nos deje fuera de algún foro el

acuerda estas cosas pero sí que nos importa el fondo de ese asunto eso sí que nos importa y eso ya se lo dijimos y se lo seguiremos diciendo y en relación con el planteamiento que el señor iturrate nos hace sobre el plan de paz y convivencia usted sabe que ese plan

usted sabe que ese plan no ha funcionado usted sabe que ese plan en principio era declarativo ya tuvo el posicionamiento de los grupos cuando fue realizado pero sabe que no tiene la anuencia que no tiene el acuerdo y que además

son más largas las distancias de los grupos parlamentarios

ha ensalzado usted una evaluación del plan en este momento en la tribuna una evaluación que se titulaba

intermedia del plan de paz y convivencia dos mil trece dos mil dieciséis

en esta materia confundirnos a todos se están confundiendo a sí mismos ese plan esa evaluación de ese plan

usted lo sabe las obsesiones de siempre gobierno central no ha querido el gobierno central la obsesión de siempre

criticando esa evaluación el papel de las asociaciones de víctimas eso sí se lo decía el otro día al lehendakari la evaluación era gobierno vasco

tan del gobierno global necesario ambicioso adelantado realista equilibrado vivo flexible participativo eso decían ustedes mismos de su propio plan y la constatación es absolutamente todo lo contrario un plan desequilibrado

y oscurantista muchas gracias barrio jauna eskerrik asko

en esta materia coincidimos y creo que es bueno que se siga manteniendo

al gobierno y al propio señor fernández que no nos gustaba el planteamiento de esa secretaría se lo hicimos llegar por escrito nuestras aportaciones y sugerencias y por supuesto me permitirá usted que nos tengamos que reservar el derecho de crítica cuando algo no nos gusta

con toda lealtad y con toda trasparencia se lo décimos aquí

no es cierto como usted dice que no se propicien homenajes es que es la finalidad declarada según el propio plan de los retratos municipales que se entregan a los ayuntamientos y que se dice ofrecido a los ayuntamientos lo dice la entrega para facilitar el impulso de actuaciones memoriales

es decir propiciar actos de recuerdo y de homenaje bien por qué se hace de esta manera se entrega a los ayuntamientos y se deja manga ancha

y si además de rondón se mete un apartado en el que se mencionan determinadas víctimas que el propio plan dice que son de carácter dudosos o necesitadas de contraste se genera una impresión equivocada de tal forma que un ayuntamiento décimo homenajeará a unos y otro homenajeará otros

y que cada cual entienda que homenajeamos a quien mejor le parezca y a nosotros nos hubiera gustado que el gobierno hubiera liderado esa política

para un relato claro y de verdad de que es lo que se pretende con esos homenajes y con esos retratos municipales no que se deje al albur de cada cual

y el del pnv otro y todos nos quedemos contentos y el silencio oculte las vergüenzas de cada cual eso no es una política de memoria clara y eso es lo que hemos querido traer nosotros aquí nosotros no hemos traído aquí este debate como usted bien sabe

de este debate hoy en el parlamento pero sí nos parece importante dejar clara cuál es su posición cuál es nuestra posición y dejar claro también qué aspectos no nos parecen adecuados

responde a los objetivos que el lehendakari expresa verbalmente con mucha contundencia y que nosotros aplaudimos

supuestamente para desarrollar algo que no corresponde con lo dicho anteriormente ese es nuestro criterio y con toda lealtad lo manifestamos aquí y el primer punto el que dice usted es que es reiterativo ustedes lo aprobaron en el mes de junio

cuántas reiteraciones le tengo yo que aguantar al señor egibar cada vez que nos trae con el señor

más que reiterativo hasta cansino y aburrido entonces le quitan ustedes valor porque hable muchas veces del derecho a decidir usted que en temas que son de amplio consenso y de calidad democrática

la necesidad de ser reiterativos en muchas ocasiones para poner las cosas en su sitio eskerrik asko pastor jauna arzuaga jaunak ez du hitzik hartu behar

señor pastor no me haga trampas porque usted ha empezado afirmando que literalmente

documento retratos que el objetivo son de actos de homenaje y luego ha leído literalmente el texto y no aparece por ningún lado el término actos de homenaje porque no es la función del documento impulsar actos de homenaje

lo que salga uno a decir aquí que nadie va a cambiar su discurso ni su prejuicio porque yo he hablado

poner en manos de los ayuntamientos herramientas para impulsar actos memoriales no actos de homenaje

durante todos los años anteriores el principio de que no es lo mismo la memoria y el homenaje que hay víctimas

tienen los mismos derechos a la memoria a la justicia a la verdad

no tienen el derecho al reconocimiento social por haber sido por ejemplo

en algo real no en una ficción que usted mismo ha contradicho en su intervención y luego dice que nosotros dejamos al albur de cada ayuntamiento pero si estamos haciendo lo mismo que hicieron ustedes qué es lo que

cuando lo impulsó el gobierno del lehendakari lópez con la señora mendia consejera en ese gobierno que por cierto denunciaba continuamente el señor maneiro o no o no denunciaba usted al gobierno lópez por dejar en manos de los ayuntamientos

está usted hablando de su voluntad de consenso de su lealtad cuando está denunciando a este gobierno lo que ustedes pusieron en marcha la actuación que ustedes pusieron en marcha el dejar en manos de los ayuntamientos el mapa de la memoria y viene a echar en cara a este gobierno que deja en manos de los ayuntamientos el mapa de la memoria que fue lo que ustedes pusieron en marcha y defendieron y defendieron

y no vinimos aquí a manipular en ni una sola ocasión

ni afear al lehendakari lópez ni a la señora mendia ni al señor ares jamás jamás

sus políticas de memoria jamás y ustedes lo han hecho y a pesarde todo como usted ha dicho señor maneiro a pesar de todo aunque

y lo ha dicho el señor pastor estamos de acuerdo y eso es lo que me duele

que estando de acuerdo en lo fundamental estén utilizando las políticas de paz de convivencia y de memoria para azuzar al gobierno para hacer oposición al gobierno cosa que no hicimos nosotros que pudimos hacer una oposición durísima y tienen ustedes

con las políticas de víctimas y de memoria jamás señora mendia y repito cómo se trabaja con rigor con coherencia y con discreción si no hay un lugar protegido al rifi rafe partidario

mire señor barrio que usted me diga

la última semana y lo que se han llevado por delante por unas palabras vamos es una humorada por lo tanto voy a hacer como si no lo hubiera escuchado es más

es que es tan cínico que usted me hable de mezclar y de que no queremos mezclar víctimas cuando

hay veintiuno miembros de eta compartiendo listado de víctimas con todo el resto de víctimas aquí lo tiene se lo paso luego seis de ellas

por la propia eta y el resto no y comparten el mismo listado sin que a usted le tiemble el pulso ni se ponga rojo señor maneiro

la construcción de la convivencia en euskadi requiere tenacidad requiere integridad requiere firmeza requiere

y usted a veces alaba esos adjetivos o alaba esos valores

donde usted ve tenacidad los demás vemos contumacia en su partido y en usted donde usted ve integridad los demás vemos integrismo

y donde ve usted un espíritu constructivo nosotros no vemos más que intención de destruir

no tiene ningún escrúpulo en mentir ningún escrúpulo en mentir en falsear en calumniar con tal de sostener sus prejuicios sí pues desde que nosotros

todo ello y usted lo repite machaconamente pero no se convierte en verdad

aritméticamente relevante muy relevante diría yo en este parlamento

pero ya van ustedes camino de ser políticamente irrelevantes aquí y en el resto del estado y

aquí más o menos con la misma o con parecida

y creo que usted no estará ahí y ese día en estos temas este parlamento será un poco más decente como le gusta a usted decir nada más eskerrik asko iturrate jauna

sí muchas gracias presidenta muy brevemente porque hay un acuerdo en relación a este tema entre la mayoría de grupos entre los grupos nacionalistas vascos

una transaccional que espero que sirva para algo y que la dirección general de e i te be atienda porque

creo que insta como corresponde a esa dirección y creo que

los mimbres compartidos entre los diferentes grupos de este parlamento es una enmienda de transacción que ciertamente contradice algunas de las cuestiones señaladas por la consejera durante la interpelación que le realicé hace quince días pero en todo caso lo importante en este caso es que hemos llegado a ese acuerdo lo que proponemos con esa enmienda de transacción es que este parlamento inste a la dirección general de e i te be a

etb como servicio público de calidad es decir profesionalidad neutralidad informativa pluralidad ideológica y veracidad y por otro lado incluir

debates conjuntos entre los partidos políticos con representación institucional y parlamentaria con criterios de profesionalidad actualidad

abordando los temas que más preocupan a los ciudadanos que es básicamente lo que yo exigía en aquella interpelación realizada a la consejera aquí presente lo cierto es que upyd tramitó una pregunta parlamentaria en su momento a la directora general de e i te be sobre las razones por las que la cadena pública

y emitir el debate periódico que durante la pasada legislatura se realizaba con los portavoces de las formaciones políticas con representación en esta cámara en respuesta

que se hubieran suprimido los debates pero lo cierto tal como yo expliqué en aquella interpelación es que los datos que ella misma aportaba contradecían esa respuesta únicamente se produjo un debate de ese tipo en concreto el día diecinueve de diciembre

recién celebradas las elecciones autonómicas y desde entonces lo cierto es que no ha habido ningún debate entre los portavoces parlamentarios venía a plantear en aquella interpelación nos parece estupendo que en esos debates puedan participar otras formaciones políticas con representación

nos parece bien pero ciertamente nos llamaba la atención que durante tanto tiempo años incluso pues este humilde portavoz parlamentario no hubiera tenido ocasión de parlamentar discutir debatir con personas tan importantes como el portavoz

u otros no había existido esa posibilidad espero que a partir de ahora pueda producirse que puedan estar si se quiere otros grupos políticos

e i te be recoja el formato anterior o semejante donde los diferentes portavoces y otros representantes institucionales podamos debatir y en su caso criticar incluso la acción de su gobierno eso es lo que nosotros pretendíamos y creo que esto al menos tratamos de salvar con el punto número dos de la transaccional que viene a ser digamos un reconocimiento por parte del partido nacionalista vasco de que

parlamentario vasco en palabras del señor iturrate tenía algo de razón por otro lado en este primer punto lo que instamos es a la dirección general de e i te be a garantizar los principios que debe cumplir etb como servicio público de calidad es decir profesionalidad neutralidad informativa pluralidad ideológica y veracidad lo cierto es que hasta ahora

y del nacionalismo vasco lo hemos denunciado bien a partir de ahora hay una mayoría

a e i te be que efectivamente garantice esos principios que al menos teóricamente todos compartimos

curiosamente he podido llegar con el señor uribe etxebarria a un acuerdo en relación

es algo novedoso espero que este acuerdo en todo caso pueda cumplirse ese es nuestro deseo

si en el momento de abordar este debate echásemos un vistazo tanto a la iniciativa original

por los diferentes grupos hay algo que queda absolutamente claro que e i te be necesita una revisión a fondo y que conviene que todos los grupos nos tomemos en serio trabajar en una reforma integral del servicio público de radio televisión

lo digo porque el proponente traía a debate una cuestión puntual que tiene que ver directamente con las garantías de pluralidad y con las responsabilidades de quienes deciden que los debates se organicen o no y de qué forma se hacen cuando se organizan los socialistas

añadimos otra la de los temas que se tratan porque para nosotros es tan importante como las personas que participan los temas que se tratan porque la pluralidad no se garantiza solo porque estén representadas todas las opciones

sino porque se hable de lo que todos los representantes públicos quieren no de lo que quieren solo los nacionalistas que es lo que viene ocurriendo en e i te be todas estas ideas están recogidas en la propuesta de reforma de e i te be

compartir con todos los grupos para enriquecerlo y profundizar en la línea que precisamente se apunta en alguna de las enmiendas presentadas

el pasado mes de mayo con la iniciativa para la creación de una comisión especial que analice reflexione y genere propuestas para una reforma a fondo del ente público vasco de radio televisión

estuvimos de acuerdo en la necesidad de afrontar ese debate y paralelamente trasladarlo y recabar la participación del conjunto de la sociedad y de los colectivos implicados porque la moción

de vista se queda corta como ya he señalado a nosotros nos preocupa tanto la presencia de opiniones que reflejen la

como los asuntos que se plantean en el debate los socialistas venimos insistiendo en que los ciudadanos quieren escucharnos propuestas sobre cómo atajar el paro cómo mejorar la calidad del empleo

y estos son problemas que realmente afectan al conjunto de la sociedad esto es lo que dicen los ciudadanos y ciudadanas

cuando se les pregunta y esto viene perfectamente reflejado en todos los estudios sociológicos pero e i te be se empeña en otra cosa en ir por otro camino yo escucho varios debates

a compañeras y compañeros que acuden más a debates y la constante es que los temas que se proponen en esos programas son los que interesan al nacionalismo derecho a decidir movilizaciones que tiene que ver con reivindicaciones de esa parte de la sociedad siempre en esa misma línea un ejemplo porque siempre es mejor poner ejemplos que hablar en genérico

en horario estelar se invitó a líderes de los partidos políticos pues bien en ese programa de estreno y con la presencia de los máximos dirigentes políticos que son personas que están tomado decisiones

los temas elegidos fueron tres uno cuestión territorial dos cataluña tres refugiados este último es claramente un tema social pero en toda una hora no se habló de crisis paro servicios sociales salvo las referencias

de los socialistas que ligo cada uno de los temas propuestos a esta realidad social pero no estaba en la idea de los responsables designados por la dirección de etb

que los responsables designados por la dirección de etb creen que debe ser

si ponemos como ejemplo el debate radiofónico semanal entre los portavoces parlamentarios queda patente que los temas que se proponen

con los temas que interesan a la parte nacionalista de la sociedad

que muestran los ciudadanos de forma recurrente cuando se les pregunta los socialistas pensamos que un medio público debe propiciar que la ciudadanía

de los diferentes partidos sobre los asuntos que más afección tienen sobre su vida cotidiana no digo que la situación política de cataluña no tenga cierto interés informativo en parte de nuestra sociedad pero puedo asegurar rotundamente que las propuestas por la creación de empleo interesan a la inmensa mayoría de los ciudadanos vascos los socialistas estamos muy ocupados y preocupados por ejemplo en hacer propuestas para crear empleo de calidad que garantice una vida digna a los trabajadores y trabajadoras

debatir eso con los demás grupos y que la ciudadanía conozca todas las propuestas y yo creo que la difusión de esas propuestas y debates

público por eso décimos que la moción presentada puede ser oportuna pero que se queda corta

está sobre la mesa el modelo de organización de los debates electorales de cara a las próximas elecciones generales asistimos a una nueva polémica sobre quiénes deben estar en unos u otros debates en las cadenas públicas está bien claro está todo dicho estamos dispuestos a contrastar posiciones con todos y nos comprometemos a impulsar la ley por ley las garantías de pluralidad y neutralidad

nuestra opinión es bien clara sí deben estar presente todos los partidos representados en el parlamento y sí deben estar todos los asuntos que todos los grupos consideremos de interés esto es garantizar la pluralidad en todos los debates y ya son varios sobre e i te be está quedando patente una opinión ampliamente mayoritaria en este parlamento como es el que tanto la línea editorial como la propuesta y tratamiento de los temas de debate beneficie claramente

y yo añadiría a los socialistas en general esta situación está fundamentada en el principio que formuló aquel dirigente abertzale que tuvo la responsabilidad del ente público e i te be es un medio hecho por abertzales a partir de ahí se ha ido generando una estructura en la cúpula que responde a ese criterio y no a lo que deben inspirar el funcionamiento de un servicio público eh bildu

de despolitizar la organización de los debates y estamos de acuerdo con ello porque la realidad nos da

se protege o se elude poner en aprieto al gobierno el martes pasado

el portavoz del gobierno aseguró que esta situación podía provocar recortes en ciertos servicios públicos pues bien ayer mismo el lehendakari es entrevistado en etb

se liquida el tema con una pregunta para salir del paso por eso como vengo señalando desde el principio cada discusión parlamentaria sobre e i te be en la necesidad de que le demos una vuelta a la forma de organizar el servicio público de propiciar una reforma a fondo esta reforma que espero seamos capaces de impulsar ha de tener diferentes niveles

y en relación con el asunto de hoy creemos que quienes aspiren de dirigir el ente

alejándole de elecciones coyunturales aumentando la mayoría exigible y por tanto el acuerdo entre diferentes en el documento que hemos presentado a los agentes sociales y a toda la sociedad proponemos prolongar el mandato de la dirección más allí de una legislatura para que no esté sometida a la mayoría coyunturales

para los puestos de responsabilidad los socialistas estamos convencidos de que esa va a ser la vía para solventar estas cuestiones no negando la realidad como viene haciendo el pnv escuchando las exigencias de trasparencia en la toma de decisiones apostando por la pluralidad

en donde se reconozcan todos los ciudadanos el debate no se acaba aquí hoy aprobaremos una enmienda transaccional que consideramos oportuna y que tiene una virtud añadida como es la constatación de la exigencia de abundar en la reflexión sobre qué modelo de radio televisión pública

muchas gracias señora presidenta y de manera breve porque efectivamente tenemos un amplio acuerdo en esta cámara pero yo creo que resulta notable porque

diferentes grupos la han puesto en cuestión en numerosas ocasiones una vez más tenemos la oportunidad de reclamar

y desde esta cámara a la dirección de e i te be y a los responsables públicos de esa casa que trabajen al servicio

que trabajen para cumplir aquellos objetivos que fijaron el rumbo que debía marcar

esa radio televisión pública vasca los principios de pluralidad de veracidad

y que siempre hemos echado en falta a una e i te be a la cabeza en la defensa de esos valores en la defensa y en la pelea por transmitir a la sociedad esos valores democráticos nos tenemos que preguntar si el encallarnos en los presupuestos de la

que como consecuencia de la interpelación en relación con ese famoso programa de los portavoces que yo realmente no sé la audiencia que podía tener aquello pero sin encallarnos en un modelo de programa o un formato determinado que seguramente con los años y los años yo creo que ya eran muchos años pues seguramente los formatos hay que revisarlos

se puede facilitar el debate político de una manera atractiva a la sociedad queremos realmente ofrecer

político nosotros entendemos que sí que la casa que e i te be debe hacerlo y que es necesario hacerlo tenemos que ofrecer

creo que lo debemos hacer queremos que tenga repercusión nosotros entendemos que sí que debe tener repercusión

que esté adecuado exactamente a lo que hoy los telespectadores vascos también esperan repercusión

no que sea un tostón eso es lo que queremos todos que tenga credibilidad

no que vayan todos no sé que día de la semana por la noche los líderes

repercusión tuvo el último debate al que hacía referencia la interpelación consecuencia de esta moción no sé veinte mil espectadores no sé dónde lo leí veinte mil espectadores tuvo

efectivamente a un planteamiento mucho más atractivo que efectivamente permita la reflexión confrontar puntos de vista

de que ahí estén representados estrictamente los representantes de cada uno de los partidos políticos

para ofrecer a la sociedad vasca de verdad una oportunidad para el debate y la reflexión de las ideas no basta con eso no basta con que tengamos que estar escuchando ahí la misma retahíla en un formato

de cada uno de los responsables políticos respetar la actualidad es no teledirigir los temas o el monotema al que se dedica e i te be

a la sociedad vasca y no estar permanentemente hablando de lo que les interesa a algunos el debate político no puede estar centrado exclusivamente en el debate que pretenden los nacionalistas esa es nuestra opinión la elección de los temas los reportajes previos claro

saber exactamente esos programas cómo se contextualizan cuáles son los reportajes previos los totales que se presentan

previa efectivamente la introducción de los temas y de las materias cómo se realizan incluso la opinión de los telespectadores o

o de las encuestas que no se sabe de dónde se sacan y que se introducen en medio de un debate respetar el pluralismo es respetar las ideas de los demás respetar el pluralismo no es pensar que en este país con que haya

no es respetar el pluralismo pensar que con dar una voz a los que no somos nacionalistas y perdonarnos la vida basta no creemos que respetar el pluralismo es respetar de verdad

saber exactamente qué es lo que pasa en nuestra sociedad y confrontar y permitir que se confronten los diferentes puntos de vista no que se maneje un punto de vista como línea editorial de una casa

y la opinión de los que no son nacionalistas aparezca como una cosa un tanto pintoresca a veces marciana ajena a nuestra realidad o a nuestro paisaje

vasca al servicio de todos especialmente cuando hablamos de debate político al servicio de la confrontación de las ideas de la crítica al gobierno

se critica al gobierno se critica al gobierno de madrid al de bruselas o al de

cuando se critica al gobierno en nuestra comunidad se tendrá que criticar al gobierno de esta comunidad pienso yo cuando se da voz a la oposición será para de verdad

y que la oposición tendrá que tener voz porque si no qué voz tienen los ciudadanos vascos cuando pretenden criticar la acción del gobierno en nuestra comunidad

nuestra televisión está para dar voz a los problemas de aquí no para dar voz a las

a la crítica cuando se trata de criticar a los demás esta televisión tiene que ser la televisión en la que debatamos cosas de aquí

a la crítica a la acción del gobierno vasco no que se pretenda utilizar esta radio televisión pública para hacer oposición a los que no somos nacionalistas

que permita discutir de una manera leal franca abrir efectivamente terrenos al entendimiento al diálogo trabajar por la convivencia desde luego
exige también empezar a cambiar las maneras y las formas de nuestra radio televisión pública nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna

yo creo que tenemos que tener en cuenta y en la propia transacción que hemos firmado algunos aspectos no menos importantes y esos aspectos se refieren con respetar la dignidad profesional de los periodistas de etb

porque afortunadamente hemos introducido criterios como actualidad interés informativo profesionalidad

tiene que regirse los periodistas en este caso los periodistas de e i te be para cumplir su función de servicio en este caso de servicio público a toda la ciudadanía vasca

ser nosotros desde aquí todos engeneral cualquier grupo ya sea económico cultural social político también de la sociedad vasca

añadiendo a todo esto esa frase de abordando los temas que más preocupan a los ciudadanos pues evidentemente pero que quede bien claro señor unzalu

no los determina el euskobarómetro ni siquiera el gabinete de prospecciones sociológicas eso es una labor profesional de los periodistas

que con criterios profesionales de actualidad y de interés informativo determinan cuáles son los temas a tratar y eso es algo que tiene que quedar muy claro porque es que no se resiste

y siempre que baja a esta tribuna da unas muestras de pretender

algo absolutamente escandaloso y yo le diría que ya vale

entre otras cosas intentar condicionar lo que es la labor profesional de los profesionales y los periodistas de etb es

desde un parlamento y desde un grupo parlamentario usted hace poco

directrices a etb y a su dirección pero es usted consciente de lo que está diciendo

le niego la mayor e i te be trata todos esos temas que usted ha enumerado y ha enunciado los trata y usted lo sabe

que es absolutamente demostrable que los trata trate otros como son el derecho a decidir el nuevo estatus la independencia cataluña escocia etcétera

y le voy a dar una prueba de que les molesta pero también con el resultado que obtuvieron eso les molestó en la legislatura anterior veníamos en una etapa que estuvo marcada entre otras cosas pero bueno dos muy importantes como fueron el nuevo estatuto aprobado por este parlamento y la ley de consulta también aprobada por este parlamento

llegan ustedes al gobierno y tienen la directriz política de decir no no aquí el único conflicto que existe es el de eta y no hay otro tipo de conflicto por lo tanto todo está bien

tiene que tener un reflejo en e i te be y e i te be lo tiene que proyectar y qué es lo que hicieron hicieron cambiar de arriba a abajo la escaleta de los gaur egun y de los teleberris

y relegaban toda la información política al minuto veinte y si era posible en breve y la hemeroteca y los archivos de este parlamento pero cuál fue el resultado el resultado fue que los informativos

perdieron su liderazgo y perdieron su primacía eso es verdad señor pastor perdieron su primacía

directriz política de que no había que tratar los temas de derecho a decidir y todas esas cosas que tanto le cansan no sé a quién a usted por ejemplo y sin embargo eso fue respondido por parte de la sociedad con

pasaron a la segunda posición perdieron el liderazgo tuvo que venir el difunto pello sarasola

cambiar la escaleta para de nuevo los informativos de etb recuperaran su liderazgo y eso es un liderazgo que se mantiene

ninguna cuestión baladí es muy importante si un medio de comunicación tiene como objetivos fundamentales el de informar entretener y formar teniendo en cuenta las exigencias de servicio público que tiene e i te be si en el ámbito de la información que no es

somos líderes desde hace meses y meses y años no es para desdeñarlo y luego ya tendremos tiempo pues de analizar otro tipo de cuestiones por ejemplo

los límites que tiene un servicio público los límites presupuestarios que tiene y bueno qué hacen otras televisiones desde luego no es mi modelo

sí gracias presidenta pretendía o pensaba que el debate iba a ser breve porque había acuerdo

el debate entre las diferentes fuerzas políticas y esto no es que se nos haya ido de las manos pero ha ido más allá de lo que uno pretendía cosa que no critico cada uno expone lo que considere el señor urruzuno

no sigue los trabajos parlamentarios de upyd eso es evidente es decir lo comprendo porque las iniciativa de upyd son abundantes no pero evidentemente esta iniciativa no surge

de que hubiera a mediados del mes de septiembre un debate donde llamaron a todas las fuerzas políticas con representación institucional salvo upyd no surge de ahí esta interpelación se registro el día diez de agosto

con ese debate nos parece bien que haya debates entre diferentes partidos políticos en los que no este

era la recuperación de una fórmula anterior en concreto los debates entre los diferentes portavoces parlamentarios en relación no lo he comentado antes a la

lo compartiría pero creo que se apartaba del tema nuclear de nuestra iniciativa y podía impedir la aprobación de lo fundamental que hoy pretendía

con algunas de las reflexiones que ha realizado el señor unzalu y el señor oyarzabal

que se tratan en e i te be efectivamente eso sí que es monotemático eso sí que es monotemático el derecho a decidir el nacionalismo los presos

eso sí que hay que cambiar y comparto también sus reflexiones en relación a la pluralidad al pluralismo y a la necesidad de articular formatos atractivos para la audiencia

e i te be escucho y veo diferentes programas de radio y televisión de e i te be por ejemplo me gusta euskadi gaztea me parece que está bien

y los presentadores son simpáticos me parece que es un programa una emisora que merece la pena y está bien procuro también ver otras cosas no solo

como no soy nacionalista no veo únicamente esos programas sino que intento ver diferentes programas para tratar de ver también diferentes puntos

los temas y los asuntos que se tratan y llama la atención que los tertulianos nacionalistas son inmensa mayoría pero seguramente llama la atención

y es que muchos de los presentadores parecen tertulianos tertulianos nacionalistas sin duda y efectivamente sino los conoces bien

quién es el moderador o quién es el presentador y quiénes son los tertulianos porque todos ellos parecen tertulianos además tertulianos nacionalistas y evidentemente eso hay que cambiar

nuevos profesionales entre comillas todos nacionalistas

son todos sus amigos son todos los amigos del partido nacionalista vasco y efectivamente no se trata de incorporar a sus amigos no se trata de que

a e i te be se trata de que se incorporen todos los partidos políticos democráticos y de que se incorporen todas las opiniones de las diferentes fuerzas políticas y de que se incorporen los diferentes temas que interesan a la sociedad pero ustedes se equivocan se han equivocado y la dirección general de e i te be

e incorpora a nuevos programas que se nos anuncian profesionales entre comillas que son todos ellos nacionalistas ayer le entrevistaron al señor lehendakari hombre

contra las cuerdas no le puso la presentadora o la entrevistadora ciertamente se le vio a usted muy tranquilo

una entrevista realizada por un profesional o una profesional

entre una nacionalista y un nacionalista y eso no es bueno pero tampoco es bueno para usted señor lehendakari no es bueno y eso evidentemente hay que cambiarlo podía contar alguna anécdota más pero lo importante quizás es que se ha firmado una transaccional

reivindicaciones en todo caso tenemos claro y seguimos teniendo claro

y la falta de profesionalidad de e i te be e i te be tiene que dejar de ser un utensilio al servicio del gobierno y evidentemente tienen que impulsarse

e i te be a día de hoy sea un instrumento sectario al servicio

sino del partido socialista que apoyó y eligió esta dirección que actualmente padecemos eskerrik asko maneiro jauna

mucho tiempo haciendo propuestas llevamos ya meses años haciendo propuestas de todas formas si usted no tiene esta propuesta que nosotros hemos repartido a toda la sociedad que le hemos repartido a todos los agentes sociales que es un nuevo modelo para e i te be se lo paso

pero en cualquier caso se lo paso para que vea cuáles son nuestras propuestas

hoy era un asunto puntual como he dicho en mi intervención y sobre ese asunto puntual nosotros hemos reiterado y hemos recalcado que lo importante es lo global que nosotros queremos discutir del fondo y eso es lo que yo creo que en mi intervención primera ha podido quedar claro o por lo menos he pretendido que quede claro queremos ir al fondo de la cuestión

tanto usted como el señor uribe etxebarria han dicho algo que a mí me ha sorprendido me ha sorprendido más lo del señor uribe etxebarria que dice

va a decir lo que le interesa a los ciudadanos pues no sé a quién preguntará usted

preguntar a los ciudadanos para ver cuáles son los asuntos que más le preocupan esa es una forma científica de hacerlo ahora si usted tiene otra forma usted suele tener ideas muy brillantes a ver si tiene alguna otra para conocer la opinión

que dice que lo que más importa a la gente lo que más le interesa es el paro que el segundo tema es

eso es lo que dice y sin embargo los temas del derecho a decidir vienen casi en el último lugar que les preocupa a un porcentaje muy exiguo de nuestra población y nosotros no queremos imponer ningún tema por supuesto que nos interesa mucho más estos temas nos interesa más solucionar el paro nos interesa mucho más solucionar los problemas económicos

tiempo como ustedes en ver el nuevo estatus político

y nos ocupamos mucho más de esos problemas que están afectando al conjunto como yo le decía no a una parte de la sociedad

efectivamente hablar de escocia o hablar

o hablar del nuevo estatus como usted ha dicho puede ser interesante puntual pero es que lo que ocurre

a los debates es que son reiterativos es que son constantes y es que no se corresponde porque si el noventa por ciento de los temas son esos y el diez por ciento son de índole económica estamos dando la vuelta a lo que son los intereses de la ciudadanía

de imponer a nadie los temas se trata de recoger aquello que más afecta a las personas que lo están pasando mal que más afecta a las personas que sufren la crisis que sufren la precariedad que hay y de todas formas mire señor uribe etxebarria usted ha firmado una enmienda transaccional

a la dirección de e i te be entre otras cosas a incluir en su programación tanto en euskera como en castellano debates conjuntos entre los partidos con representación institucional y parlamentaria con criterios de profesionalidad actualidad e interés informativo abordando los problemas que más preocupan a los

a la dirección a que lo haga quiere decir que no lo hace que usted mismo reconoce que no lo hace

usted ha afirmado que insta a que se haga no tiene usted muy claro que eso se hace

esta enmienda tengo claro que he instado que instamos a la dirección porque no lo hace porque lo tiene que hacer y usted ha hecho lo mismo

muchas gracias señora presidenta pues efectivamente teníamos un acuerdo pero aquí cada uno

sus posiciones pero bildu no ha firmado este acuerdo todos los demás sí y yo me alegro que el pnv haya firmado un acuerdo porque efectivamente yo creo que es

más competitiva pero también sobre todo mucho más preocupada por esos valores esos aspectos de los que antes hablábamos bildu no lo ha firmado porque echaba de menos medidas concretas nos decía yo creo que esta cámara

no se tiene que dedicar a darle a la dirección de e i te be el formato preciso ni las pautas

realmente lo que nos ha dicho y es lo realmente importante y es lo que creen es que ellos una televisión al servicio de su proyecto político del independentismo vasco sí de la ruptura de nuestros marcos de convivencia y finalmente de la construcción efectivamente de ese

y lo dice aquí y sin despeinarse y eso es lo

de lo que debe ser e i te be y lo malo no es que lo diga usted sino que lo piensan muchos profesionales de la casa

por llamarles de alguna manera pero es verdad que lo piensan muchos profesionales de la casa y realmente ellos creen que

la responsabilidad hoy de la dirección de e i te be es efectivamente contrarrestar

una manera sectaria de entender los medios de comunicación al servicio de

no entienden lo que tiene que ser hoy una radio televisión pública democrática yo creo que la responsabilidad hoy y yo

en esta enmienda del partido nacionalista vasco es que comprenden que su labor su responsabilidad es contrarrestar a quienes creen

vasca tiene que estar al servicio de unos y que entienden realmente que es una televisión al servicio de todos y que se debe trabajar y que debemos trabajar cada día

y una radio al servicio del conjunto de la sociedad yo

hay muchas cosas que discutir y seguramente muchos puntos de vista a la hora de afrontar este debate y seguramente muchas cosas de las que discrepar

una mayoría que nos pongamos de acuerdo en que hay algo que hacer hay algo que hacer y además hay algo que hacer porque además no solo por defender esos valores sobre los que se tiene que fundamentar la radio televisión pública vasca la e i te be

con la que se pueda sentir identificada una mayoría de la sociedad yo no me siento identificado pero

el señor gorka maneiro pues está muy pendiente de lo que pasa en e i te be yo

casi el noventa por ciento de la sociedad vasca estoy poco poco pendiente

porque yo pensaba que queríamos una radio y una televisión pública vasca

de proximidad para hablar de las cosas que pasan aquí para que efectivamente si hay unas instituciones aquí pues hagamos crítica aquí oposición oiga pues para criticar al pp pues los vascos tienen la uno la dos la tres la cuatro la cinco la seis e i te be qué aporta

creíamos que e i te be tenía que ser un instrumento y seguimos pensando que e i te be debe ser un instrumento es imprescindible que sea un instrumento en la construcción de nuestra convivencia

de una comunidad en la que se nos respete a todos respetarnos a todos es respetar las ideas de todos

respetar el pluralismo una televisión que realmente pueda servir para transmitir que esta sociedad no es lo que quieren estos señores que

ez dut uste egongo direnik yo coincido con el señor

yo creo que esa es la vocación y eso es lo queremos y eso es lo que pretendemos pero

hay colores y a mí también me han venido voces diciendo que yo no lo vi

nahieran perdón pero a mí me dijeron que había sido rigurosa y dura

la presentadora efectivamente sí me habían dicho

cada cual lo puede ver como crea conveniente o sea que a partir de ahí sobre gustos no hay nada escrito

absolutamente todas y creemos que e i te be

lo que hace es proporcionalmente reflejar en sus medios y transmitir al servicio de la opinión pública vasca lo que es actualidad

de interés informativo con la mejor honestidad profesional que pueden la mejor honestidad profesional que pueden yo

si usted fuese jefe de la sección política de e i te be qué es lo que haría todos los días cuando llegara allí a las nueve de la mañana llamar al señor llera a ver qué temas iban a introducir en la escaleta del teleberri o del gaur egun qué iba a hacer el euskobarometro

es un estudio que se realiza si no recuerdo mal cada seis meses la muestra y todo bueno podemos discutir entonces para ustedes es la biblia que no

se forman para eso para trabajar con honestidad profesional para detectar lo que es la actualidad lo que son los hechos de interés informativo y que pueden contribuir al buen desenvolvimiento de los ciudadanos a los que se dirigen

porque a su servicio están a mí me parece muy importante y se lo digo muy en serio señor unzalu

cuáles son las bases y la esencia de la profesión periodística porque si no se pueden cometer enormes errores enormes errores de intento de teledirigir esa labor hay que entenderla muy bien

pero por favor un poquito de respeto de respeto a los profesionales de e i te be en su labor

para toda la sociedad hay que respetarlos y

pero especialmente nosotros termino parafraseando

decía el señor maneiro que ve la radio bueno parafraseando un poco

es invisible a los ojos y que si no es con el corazón las cosas no se ven bien eskerrik asko